lo cierto es que el grupo socialistas vascos el señor

con su moción que instemos al gobierno vasco a remitir a esta cámara el cálculo de lo que supondrían las nuevas figuras tributarias sobre la previsión de ingresos

entre ellas las relacionadas con la actualización de balances de empresas recargos sobre la producción energética y el juego esta moción del grupo socialistas vascos surge como consecuencia de las dudas que este dice albergar sobre el capítulo de ingresos del proyecto de presupuestos recientemente presentado por el gobierno vasco según la teoría socialista según la teoría

el gobierno vasco podría haber elaborado un proyecto de presupuestos

lo cual nos habría permitido enfrentar mejor la crisis económica salvaguardar mejor el estado del bienestar e impulsar con ello la actividad económica y el empleo el grupo socialistas vascos lo ha puesto de manifiesto otra vez el señor

en la interpelación de la semana pasada sospecha que el gobierno actual juega con los ingresos para quizás sacarlos más adelante

y ganarse el calificativo de buen gestor el señor iturrate ayer mismo parlamentario del partido

interesante digo que ayer mismo respondía al grupo socialistas vascos lo siguiente

el proyecto deriva del resultado de la reunión del pasado octubre del consejo vasco de finanzas donde están representados gobierno y diputaciones forales y añadía que es

del partido socialista de euskadi entonces ya en funciones y bildu a través de la diputación de gipuzkoa pretendan denunciar que es este gobierno el que renuncia a unos ingresos superiores así las cosas el grupo nacionalistas vascos presenta una enmienda de totalidad a esta moción planteada por el grupo socialista que viene a recordar que es el consejo vasco de finanzas quien fija los ingresos de los que disponemos

del consejo del próximo octubre reunión en la que se concretaría la previsión de cierre de la recaudación anual digamos que esto es un poco

trata de relatar los hechos hasta ahora digamos que entre medias

para recordar que todo este lío es producto del entramado institucional y fiscal que tenemos los ciudadanos vascos entramado institucional y fiscal que nosotros

decir en este asunto una comunidad autónoma de apenas dos millónes de habitantes con cuatro parlamentos tres haciendas forales tres políticas fiscales

la circunstancia de que el máximo órgano representativo de la ciudadanía esto es este parlamento puede decidir sobre los gastos pero no sobre los ingresos además de la existencia del concepto económico el cupo etcétera etcétera

es el consejo vasco de finanzas el órgano encargado de fijar el nivel de ingresos del que dispondremos y es también un hecho cierto que en su última reunión de octubre

y es también verdad que en esa reunión ni la diputación foral de gipuzkoa ni el gobierno socialista en funciones se opuso a este nivel

dicho esto también es verdad que este es un debate más político que técnico y que lo que reclama el grupo socialistas vascos es información en concreto

propone que instemos al gobierno vasco a remitir a esta cámara el cálculo de lo que supondrían

quizás faltaría preguntarse si esta previsión de ingresos para dos mil trece podría elevarse también como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal nosotros sí pensamos que ahí tendríamos margen de maniobra cabe señalar también que la previsión de ingresos por supuesto debe ser rigurosa y cierta y nunca en ningún caso puede recoger datos falseados que tengan como objetivo final engañarnos a nosotros mismos

a los ciudadanos ya el señor bilbao planteó en enero de dos mil trece que se han producido cambios normativos en diciembre que podrían justificar esa revisión de las previsiones el propio señor bilbao admitía entonces que también hay factores negativos

que las que se manejaban en octubre por su parte tanto la diputación de álava gobernada por el pp como la diputación de gipuzkoa gobernada por bildu

algo que terminó siendo fundamental para que el gobierno actual y el señor bilbao aparcaran el asunto es obvio que no basta con desearlo para poder tener más ingresos desde luego se podría impulsar y aprobar una reforma fiscal para tener más ingresos

pero también podemos adoptar un mayor compromiso en la lucha contra el fraude fiscal para tener más ingresos en dos mil trece y desde luego como venimos reclamando desde

gastar mejor para gastar menos pero para gastar mejor suprimir gastos superfluos y eliminar duplicidades y de ese modo y con esos recursos liberados poder destinar nuevos recursos a defender la educación

e impulsar más y mejor la actividad económica algo que efectivamente este proyecto de presupuestos no hace voy concluyendo lo cierto es que el gobierno actual decide ya este año no efectuar una modificación al alza de las aportaciones previstas en octubre del dos mil doce no era conveniente a efectos de negociaciones presupuestarias posteriores es decir la decisión del gobierno actual es una decisión claramente política

tal como se ha dicho que los ingresos serán finalmente mayores que los presupuestados y ahí

hemeroteca suficiente de la que podríamos echar mano para poder recordarlo y comprobarlo y para terminar

el señor lehendakari me contestó a mí mismo desde esta misma tribuna hace una semana

es cierto que podremos contar con nuevos ingresos a lo largo en conclusión y para terminar y teniendo en cuenta todo esto upyd votará finalmente a favor de la moción planteada por el grupo socialistas vascos para que el gobierno

el cálculo de lo que supondrían las nuevas figuras tributarias sobre la previsión de ingresos para dos mil trece y lo haremos para defender más claridad y más transparencia

que me ha sorprendido y venía a hablar de su propuesta

pero visto que nadie habla de su propuesta ni siquiera usted mismo pues hablemos todos de lo que todo el mundo habla porque usted aquí nos ha traído

que el gobierno vasco remita a esta cámara el cálculo de lo que supondrían las nuevas figuras tributarias sobre la previsión de ingresos para dos mil trece entre ellas las relacionadas con la actualización de balances que luego usted nos ha dicho que ya lo conocen todas las diputaciones y lo conoce todo el mundo por eso nosotros queríamos preguntarle a usted por qué pedía algo que ya se sabe cuánto es y cuánto está cuantificado por todo el mundo y usted debiera de saber

que con estos supuestos mayores ingresos tenía menos ingresos y por eso alguna diputación se oponía

que se pueden concertar a lo largo de la legislatura yo le voy a decir una cosa mientras ustedes han gobernado aquí y allí no han concertado nada

si me tengo que atener a lo que ustedes votaron en el pleno de fiscalidad en el cual reclamaban que se concertara la normativa le diré que la posible recaudación por ese concepto va a ser cero porque nosotros nos vamos a oponer y como usted sabe esto es cosa de dos es decir la concertación

y nosotros ya dijimos que estábamos en contra de concertar la normativa ustedes estarán a favor ahora que no gobiernan en ningún sitio pero nosotros seguimos pensando que este tipo de impuestos

no sé si ustedes cambian cada semana en estos conceptos pero nosotros no

que la previsión de concertación de ingresos si no varían las posturas de los gobiernos va a ser cero si ustedes quieren votar en contra del presupuesto no hace falta que se inventen motivos

y no hace falta que nos venga aquí a contar esta historia que nos ha contado le voy a recordar

le voy a recordar la previsión para el año dos mil doce que se hace en octubre de dos mil once sin tener en cuenta las subidas del irpf de diciembre sin tener en cuenta las subidas del impuesto de patrimonio

eso sí con una previsión de incremento de recaudación pero sin tener en cuenta todo eso y sabe cuál fue el efecto menor recaudación

se recaudó menos pese a que subieron los impuestos algunos no previstos

que haya nuevas figuras impositivas el que se suban determinados impuestos no implican que se recaude más

previsión es eso previsión y cuando hablamos de presupuesto se presupone pero ustedes también lo hacían

es a santo de qué aprovechando que usted pedía algo que por cierto lo podía haber pedido por escrito y si cuando empezó a redactar la interpelación para venir hoy aquí

si tanto le importaban esos datos que al parecer y oído su discurso no le han importado lo más mínimo pero lo que yo no le puedo admitir a usted es que nos venga a decir aquí hoy que es que el objetivo de déficit nos lo tenemos que saltar y es una imposición oiga es una imposición suya

si es lo que ustedes pactaron pero qué discurso nos viene a hacer usted aquí

gobernando si están en desacuerdo con lo que ustedes pactaron mientras gobernaban salgan aquí y nos lo digan y planteen modificar lo que han hecho ustedes mientras han gobernado aquí y en madrid pero no venga diciéndonos que la culpa es de los demás y que hay que revelarse contra el psoe habrá que revelarse

aquí y en madrid eso es lo que nos ha venido a plantear el señor prieto hoy y que hay que incumplir ese es su discurso hoy

somos partidarios de cumplir las normas siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo cuando no nos gustan procuramos intentar cambiarlas en función de los votos que tenemos lo conseguimos

pero le voy a repetir una vez más el que se pueda contar con nuevos ingresos no significa que se pueda contar con más ingresos de hecho cuando ustedes gobiernan contamos siempre con menos ingresos que es lo que ha ocurrido hasta ahora y es cuestión de ver solo números

cuestión de ver solo números repito yo venía a hablar de lo que usted pedía

después de su intervención que evidentemente le da absolutamente igual lo que usted pedía porque ya nos dice que incluso las diputaciones ya lo saben hace tiempo pues por lo tanto pues si a usted

el problema no es la constitución si se reformó o no el problema no es los gobiernos socialistas

euskadi el problema no son las declaraciones que se puedan hacer hoy o ayer por uno o por otro el problema es

o tapar con palabras lo han creado ustedes solamente ustedes vamos a ver

el señor bilbao propuso la revisión al alza de los ingresos fiscales al considerar

por la activación en los últimos meses de figuras fiscales relacionadas con la actualización de balances de las empresas con los impuestos energéticos y con los del juego oiga señora gorospe si le quiere echar la bronca a alguien por hablar de impuestos concretos

al diputado foral de bizkaia que ha hablado de los tres impuestos

del de la actualización de balances y del de la energía y que yo lo repito aquí pero que

del asunto no es el partido socialista es él luego céntrese sepa de qué está hablando yo estoy hablando del problema que han creado ustedes que ha creado el partido nacionalista vasco

hace estas manifestaciones es que días después ricardo gatzagaetxebarria dice que está de acuerdo con el recálculo y que de aprobarse supondría doscientos millónes más para las diputaciones y cien millónes más para las diputaciones y para los ayuntamientos oiga échele la bronca al señor gatzagaetxebarria porque igual no sabe lo que dice

el señor erkoreka aquí presente se puso a defender la propuesta en esos mismos días

en función de unas reformas que tuvieron lugar después del cálculo que se hizo en octubre del dos mil doce del famoso consejo vasco de finanzas de octubre del dos mil doce oiga que es el señor erkoreka quien lo ha dicho oiga

pero a mí qué me cuenta a mí qué me saca la constitución o a zapatero

actualidad está el único que le ha faltado decir para tapar el problema de fondo

el lehendakari de todos los vascos y dice es cierto que podremos contar con nuevos ingresos

esto va de fraude esto de qué va este es el problema oiga que ustedes presentan un presupuesto el doce de marzo que provocan que haya una revisión o un recálculo llámenle como les dé la gana

lo tapan de cualquier manera y no quieren que se les pida cuentas por esto

la política derivada de recortes de no querer hacer un cálculo correcto oiga pero ustedes en qué país viven qué política es la que quieren hacer yo entiendo la posición del señor damborenea y de la señora pinedo defienden otros intereses el del álava

pero no es ese el debate haya cuidados con cuáles son las repercusiones

el problema es que aquí el grupo socialistas vascos le dice

y le dice a esta cámara que queremos que ese recálculo del que ustedes han hablado lo han precisado le han puesto los títulos le han puesto los nombres

que salga porque no es de recibo que sabiendo que esos recursos están y que todos ustedes dicen que están no estén en los presupuestos y que como consecuencia de que no están en los presupuestos

oiga ustedes están satisfechos con esto oiga están felices con esto están contentos creen que esto es un problema de

quince minutos hablando y de utilizar con más o con menos acierto

o esta cámara está ante el emplazamiento y ante el problema de gobernar esta sociedad y en la medida que tiene que gobernar esta sociedad de devolverle a esta sociedad en políticas económicas en políticas sociales en políticas presupuestarias lo que esa sociedad requiere necesita y demanda ese el problema y ustedes han presentado un presupuesto trucado

un presupuesto trucado en los ingresos y a continuación van a una política infame no sé si se puede decir más claro infame porque la política de gasto es recortar a diestro y siniestro

en las políticas de empleo en las políticas sociales en todas pero si se lo dicen los suyos si lo dice la señora guereñu

para decir sí o no a los presupuestos si ustedes mismos dicen que son malos

y sabe lo que se está haciendo este es el problema oiga ya está bien de echar la culpa al empedrado

reaccione lehendakari reaccione pongan los recursos de los presupuestos

esta comunidad los dineros que se pueden gastar ponga esos y así no someterá a esta comunidad a unos recortes infames hágalo eskerrik asko prieto jauna

no tiene más que enfrentarse con una sonrisa nosotros estamos centrados

de centro y humanistas por eso la persona está en el centro de todo lo que nosotros hacemos y se ha visto claro en el proyecto del presupuesto con todo lo que se destina a gasto social precisamente por eso yo señor

porque si usted refuerza el argumento y si usted tiene un argumento de peso no va a tener necesidad de

como la que usted aquí nos ha hecho la verdad es que cuando uno o una defiende algo tener un argumento sólido propio a poder ser la postura del partido que una defiende

suele facilitar mucho la tarea cuando todas y todos los que estamos en esta cámara bajamos aquí y creo sinceramente que eso es lo que ha ustedes les falta les faltan argumentos de peso

dejando lo que han dejado haciendo lo que han hecho justificar lo que ustedes pretenden hacer maneiro

usted hablaba de los ingresos superiores a los presupuestos como en mi primera

si hubiera ingresos superiores como en otras ocasiones se ha hecho se incorporarían también y habría proyectos de los cuales se beneficiaría

todas las vascas y todos los vascos como otras veces se ha hecho como ya le he dicho antes

inyectando doscientos cuarenta y nueve millónes en la revisión de la previsión de la recaudación en el presupuesto del dos mil diez que lo hicieron los socialistas por tanto es algo que

el resto de impuestos gure zuzenketan argi eta garbi esaten da de la eventual concertación de aquellos ingresos que pudieran derivarse

de la eventual concertación de algunos impuestos lo pone clarísimamente clarísimamente lo han manifestado en todas las ocasiones en que han hablado distintos portavoces del partido nacionalista vasco bien quien ha hablado en nombre de la diputación foral de bizkaia bien quien ha hablado en nombre del gobierno vasco siempre se ha manifestado clarísimamente son ustedes

quienes dejaron todos los deberes sin hacer son tantos que en cincuenta segundos soy incapaz de volver a repasar todos los deberes que dejaron sin hacer todos los ingresos que dejaron sin negociar

interpretación que había que no fueron capaces de hacer además de

de deuda ya les hemos dicho flexibilidad en el déficit ustedes lo podían haber negociado discrepancias en la interpretación

la ley del cupo o haber dado pasos para ello haber concertado los tributos en aquella época

de escenificaciones cuando a ustedes les conviene no cuando tienen razón no obstante

adquirió un compromiso en esta cámara personal del gobierno y nosotros como grupo parlamentario que avalamos y apoyamos su gestión hacemos propio seguiremos trabajando para llegar al acuerdo

grupos parlamentarios el gobierno

y también el partido nacionalista vasco seguirá haciendo lo mismo para llegar a acuerdos entre distintos partidos porque la situación lo requiere

muchas gracias señora presidenta señor prieto usted sabe

que hoy todo presupuesto tiene dos techos el de los ingresos y el del déficit esos dos techos hoy cuentan con la aprobación del partido socialista de euskadi

sí señor prieto uno en el consejo vasco de finanzas de octubre

sí sí y otro con el señor zapatero en cuanto al déficit

lo sabemos todos perfectamente lo sabemos todos perfectamente hubo un acuerdo en el consejo vasco de finanzas el gobierno vasco tiene tres representantes tres

ahora usted dice se puede contar con más ingresos a lo largo del ejercicio sí

claro que se puede y con menos y con menos que es lo que los últimos años nos está ocurriendo y con menos y por eso está el consejo de octubre para ver la previsión de cierre que también es previsión cómo se hace y lo sabe usted tan bien como yo lo que no puede ser es que usted nos venga a decir aquí nuestra postura el pp tiene esta postura porque el que defiende álava yo lo que no le entiendo es a usted

solo beneficiaba a dos administraciones que iban a contar en su presupuesto con más dinero

a costa de otras dos administraciones que iban a contar con menos dinero yo no sé si para usted los alaveses no son vascos por lo menos de momento evidentemente nosotros cuando alguien plantea podemos tener unos mayores ingresos y casualmente solo los tiene él

si el inteligente personaje que plantea eso a usted le logra convencer los alaveses

venía aquí a discutir sobre una moción de solicitud de información y lo he dicho en mi intervención en el primer punto o me he equivocado de mes o esto era el inicio del debate presupuestario y que yo sepa el debate presupuestario no es hoy si se trata de poner frente a frente la actitud del partido que sustentó el anterior gobierno vasco

pero aquí veníamos a hablar de una moción en la que lo único que se hacía era pedir una información y de ahí al debate presupuestario hemos dado un salto triple pirueta y hemos acabado debatiendo sobre el déficit pues bueno debatiremos

sobre el proyecto de presupuestos presentado el otro día por el gobierno del señor urkullu ya hemos aclarado

y lo que visualizamos y desde nuestro grupo hemos dicho que creemos que hay otras vías de buscar ingresos pero sinceramente creo que hoy

hoy solo había una solicitud de información y esa solicitud de información

lo que esa información el efecto que pueda o deje de tener o pueda tener o deje de tener esa información

por un principio de prudencia es que no va a ser hoy es que estamos hablando y lo he dicho en mi intervención anterior estamos hablando de que el año pasado se recaudaron setecientos millónes de euros menos de lo presupuestado y el año anterior

vamos a ser un poquito prudentes con las cosas y hasta ahí tendríamos que llegar pero sinceramente el debate presupuestario es dentro de dos meses mes y medio

pero de momento no es el debate presupuestario señorías eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta nosotros vamos a votar en contra de la propuesta inicial que lo que plantea es que kutxabank desaparezca

intervenga kutxabank y queremos que siga vamos a votar en contra directamente de su propuesta inicial respecto a las otras cosas que usted planteaba

simplemente le tenemos que decir que las acción social de las cajas está muy bien pero se basa en los beneficios de kutxabank y si kutxabank deja de tener beneficios

como también nosotros eso lo tenemos muy claro y tienen ustedes presentada otra propuesta en esa materia y en ese sentido lo discutiremos más adelante no es una ong

de ahorros de cada territorio hagan la obra social y sin beneficio no hay obra social y sin beneficio

y las cajas por si no se han enterado ustedes todavía cómo funciona esto

entonces por lo tanto hemos llegado a una enmienda de transacción con el grupo nacionalista en el que no solo a kutxabank sino a todas las entidades porque como ustedes reconocen hay más

que apoyen al desarrollo a la economía real y a las empresas y se impulse el modelo productivo del país vasco y se apoye también como no puede ser de otra manera a empresarios individuales y a microempresas y que por cierto es donde un banco puede tener

su mayor parte de negocio evidentemente como nosotros tampoco pensamos que

es un instrumento ni necesario ni no necesario para conseguir las soberanía como se lo ha dicho el representante de eh bildu pues qué quiere que le diga

pero es evidente que nosotros kutxabank es un banco que evidentemente es público porque actualmente el cien por ciento del capital está en manos públicas y ya veremos al final

adibidez kutxabank pide al gobierno facilidades para reabrir el grifo

kutxabank pide al ejecutivo central una regulación estable para que pueda fluir el crédito a las empresas agerian uzten dute euren asmoa

seikoa kutxabank destina siete millónes a su plan para hacer frente a los desahucios

otsailaren hemeretzikoa kutxabank dará su apoyo a la política económica del gobierno

queremos nuestro propio modelo financiero un modelo que tenemos que en un contexto de crisis financiera en un contexto de crisis bancaria internacional

han sido solventes han sido rigurosas comprometidas con el entorno claro que sí como siempre lo han estado y sobre todo han actuado con principios y nosotros esperamos que siga siendo así euskal herritarren ongizatea eta segurtasuna

sí gracias presidenta voy a ser algo más breve que la señora gorospe

presidenta señorías yo he venido a este asunto con la intención de escucharle

las explicaciones sobre esta iniciativa y para saber si de sus explicaciones se podía

de lo que realmente se plantea aquí aunque bien es cierto que lo que se somete a consideración de esta cámara son los cuatro puntos de su iniciativa y la verdad que en las explicaciones que ha hecho pues bueno hay un montón de consideraciones que podemos compartir

no dejan de crear una dificultad a la hora de adoptar una posición sobre su iniciativa sobre la parte dispositiva de su iniciativa porque para mí es una moción realmente confusa

y de ahí que no sé si tiene esto alguna capacidad de arreglo pero la verdad es que no tenemos ninguna motivación para poder apoyar una iniciativa de este tipo por lo siguiente en el punto primero habla

con el apego al territorio entre otras cosas porque kutxabank opera en quince autonomías de las diecisiete en quince de las

en su volumen de negocio y en su capacidad de actuar para después poder producir beneficios y poder hacer obra social tiene una extensión extraordinaria

en su primer punto esto se concreta hacia algo que tenga una visibilidad para que esta cámara se pronuncie en el punto dos habla de dar prioridad a una política de crédito suficiente y duradera y esto está muy bien pero

cómo se manifiesta de verdad para que los ciudadanos después del debate de esta iniciativa si se aprobara vean

ha tratado de intervenir sobre algo concreto para resolver un grave problema que hay que efectivamente es la falta de crédito pero claro esto además tampoco es algo que debamos de pedírselo solo a kutxabank sino

esto es transversal esto es a todas las entidades financieras todas con independencia de que unas dediquen sus beneficios al lucro y otras dediquen el beneficio

desde el punto de vista una función pública desde el punto de vista de lo que significa la banca la banca es un instrumento para poder facilitar mediante el crédito mediante el manejo del dinero necesidades

etcétera todas las entidades financieras están exactamente igual de obligadas y de exigidas a que hagan funcionar el crédito todas tienen que cumplir con esa función es para lo que existe la banca sino no tendría ninguna razón de ser las entidades bancarias

vemos además de esa carencia esa falta de concreción si realmente ustedes detectan un problema

yo estaría a favor de hacer un acto concreto de resolver algo en concreto de que el punto dos fuera un punto en el que dijera esto es lo que hay que hacer

que tampoco me aclara su iniciativa en el punto tres

objetivos ocultos identifique los objetivos ocultos cuáles son esos objetivos ocultos si realmente son hay objetivos ocultos que

no son desde el punto de vista político desde el punto de vista social asumibles aceptables se identifican nosotros viendo la naturaleza de los mismos podremos pronunciarnos podremos decir algo pero usted

y esto impide que ese punto tercero tenga un destino sepamos a donde quiere llegar en el punto cuarto plantea que kutxabank renuncie a aplicar legislaciones y normativas extrañas lo mismo que el punto tercero

si este parlamento ha de hacer un acto en contra de determinadas posiciones legislativas tendrá que hacerlo sabiendo

y esto como le digo no se plantea nos pasa exactamente igual con la enmienda transaccional que ha planteado el partido popular y el partido nacionalista vasco está bien es una enmienda que lo mismo sirve para un día que haga frío que para un día que haga calor

no tiene ninguna concreción son generalidades que todas las entidades financieras hagan lo mismo perfecto que todas den crédito estupendo que todas hagan obras sociales estupendo

para eso la mejor conclusión de la transaccional hubiera sido

todos un abrazo eskerrik asko prieto jauna

entre una entidad financiera y otras no sé si para ustedes

pública o privada ni como opera ni qué hay que exigirle yo si sé lo que es kutxabank y desde luego no es una entidad pública

es un banco sa tiene tres accionistas que son tres cajas de ahorros

lo hacen con los dividendos que reciben de ese banco sa

gran parte de sus beneficios fuera de estos tres territorios o de estas tres provincias entonces no entiendo cuál es su discurso

no lo entiendo en absoluto tampoco entiendo cuando usted nos habla de las hipotecas qué nos está planteando que kutxabank

yo digo por ponerme de acuerdo con usted y aquí no pagamos nadie así de claro que está planteando

qué nos está planteando no hay que cobrar o a unos sí y a otros no

a mí me gustaría saber si aquí podemos dejar de pagar todos

ahora lo que no le voy a admitir a usted es que usted me venga a decir que es que la ley hipotecaria mata y se producen

mire yo no quiero reiterarle los debates que estamos teniendo aquí yo no sé si hay alguna responsabilidad permítame que lo dudo en que una ley salvo las leyes que plantean la pena de muerte en determinados países

que los responsables de la muerte de alguien salvo que sean suicidios y además también es posible que haya alguien siempre hay responsable

nunca es una responsabilidad etérea de una ley del entorno de la sociedad que son las excusas de quienes no asumen sus responsabilidades propias incluso en las muertes ajenas

a mí no me vuelva a sacar este tema porque si quiere hablamos de los muertos

me dice usted que es una institución pública como tal institución pública usted tiene cierta contradicción

cómo puede plantearse a lo mejor rebajar sueldos o cómo puede plantearse a lo mejor reducir el personal

cómo puede planteárselo no claro está para perder dinero pero luego usted además quiere

que la cuenta de resultados del banco sea mayor cada año y luego vamos a dejarnos de hacer trampa aquí en una cosa las cajas vascas han estado fenómeno gestionadas mire usted si no se hubiera hecho esto una de las tres hoy estaba intervenida así de claro

ni obra social ni contratos laborales ni contratos con empresas apegadas al territorio y también le quiero decir una cosa usted mismo ha reconocido en el momento inicial

suponen el cincuenta por ciento más o menos de la cuota de mercado en el país vasco usted cree que va a ir a más o que va a ir a menos usted cree si de verdad le importa la obra social el beneficio

usted cree que kutxabank va a sobrevivir incrementando su cuota de mercado en el país vasco usted cree que va a ocurrir eso

usted se está planteando de verdad eso usted nos está viniendo a decir aquí

con empresas radicadas en el país vasco y con el resto no quiere usted que el resto haga lo mismo con kutxabank quiere saber cuál sería el beneficio y la obra social de las cajas de ahorros vascas o que demagogia ha venido a hacernos usted aquí hoy

eso es lo que ha venido a hacer demagogia con kutxabank haga la demagogia que quiera

por toda españa y si puede además fuera que tenga muchos beneficios y que con esos beneficios las cajas vascas puedan hacer mayor

y al señor txarli prieto pues si quiere nos damos un abrazo

señor isasi yo comparto una filosofía que de alguna forma usted la planteaba aunque la planteaba con otros términos la ley es muerta el derecho es vivo

que derivan en actitudes antisociales antieconómicas antinterés colectivo

antinterés servicio público o interés colectivo de la sociedad

yo estoy abierto el grupo socialista está abierto a las iniciativas de cualquier grupo que pueda incidir en ese tipo de cosas si usted me está planteando aquí

propuesta que hay que hablar más de las subordinadas que hay que hablar más de los desahucios que hay que hablar más de las líneas de crédito del precio del dinero de las políticas de provisiones de la obra social de los vitalquileres y compañías si usted quiere hablar de todo eso nosotros estamos dispuestos a hablar de ese tipo de cosas

nosotros estamos tratando de buscar una mayor concreción en los actos políticos que haga este parlamento porque al fin y a cabo cuando salimos de aquí deberemos de dar explicaciones de las cosas que hacemos entonces si iniciativa que sustituye su terminología un tanto confusa nada concreta por acciones o propuestas concretas las vemos y entonces esos campos y en otros muchos más nosotros estamos totalmente

pero queremos que se vaya a la concreción queremos que se vayan a los asuntos que tengan una identificación social una identificación económica y no solamente con kutxabank con todas las entidades financieras con todas las cajas y con todas las entidades financieras porque la política intervenir para el conjunto de las actividades públicas que se hacen en la sociedad y por lo tanto hay que meterlas

esto es lo que no existe en su iniciativa usted ha intentado explicarlo y razonarlo de otra manera hay partes de su razonamiento que están bien pero luego no tienen una

iniciativa y esto es lo que habrá que abordar en otro momento de otra forma pero con lo que nos ha planteado aquí es tan insuficiente y tan extraño ya que ese término aparece en su propia iniciativa que no le podemos acompañar no podemos apoyar esa iniciativa y luego

usted tiene una enmienda transaccional no ha dicho ni pamplona sobre ella no la ha defendido

absolutamente nada de ello porque en realidad su enmienda transaccional es más bien una plegaria y como usted sabe una plegaria que es un rezo

pues no deja de ser una petición de protección de ruego de ayuda y la verdad que si usted se dedica a traer aquí plegarias